barrera ocerin maría victoria de iturrate ibarra maite

que ya son unos años en los que la juventud de este país está sufriendo más para intentar tener una vida digna pero estructuralmente siempre han sido un colectivo al que no le ponemos en el lugar que le toca ocupar la juventud es el futuro de la sociedad y como tal es de deber apostar por ella

a mi generación se nos decía que estudiáramos para poder tener un futuro digno

que si estudiábamos una carrera o un grado superior tendríamos

sin embargo eso hoy en día no está siendo verdad en la generación más preparada que hemos tenido nunca en euskadi observamos como el paro juvenil

no hay duda de que en tiempos de recesión económica los contratos de trabajo y el número de desempleados aumentan en toda la sociedad pero no podemos olvidarnos

que para la juventud estos periodos son doblemente problemáticos no solo son el primer objetivo de los recortes en los empleos sino que además su transición del sistema educativo al mercado de trabajo se convierte en algo casi imposible así la nueva situación de la juventud se caracteriza por la dificultad en la transición desde la vida académica a la profesional

un retraso en la emancipación solo el cuarenta y ocho por ciento de nuestros jóvenes se ha emancipada y la edad media para dar el paso son los treinta años a pesar de que la propia juventud vasca

sin embargo en europa la edad media para independizarse son los veintiséis

se reduce considerablemente es el caso de dinamarca por ejemplo donde los jóvenes se van de casa a los veintiuno y solo el dieciséis por ciento de los mismos vive con sus padres

director de juventud del gobierno vasco afirmó en dos mil quince que en euskadi el principal problema que dificulta la emancipación es el desempleo

para dar este paso porque además las condiciones laborales de la juventud vasca en general tampoco propician la salida del hogar paterno ya que predominan los contratos temporales y han aumentado los trabajadores a tiempo parcial que hace que la juventud acepte jornadas reducidas porque no encuentran empleos a tiempo completo y como los datos así lo demuestran

ahora mismo no se puede obviar que entre los trabajadores jóvenes impera el empleo precario y de baja remuneración dificultando

el proyecto de vida de lo que hoy en día se conoce como la sociedad de la incertidumbre o del riesgo el catorce de noviembre de dos mil trece se debatió en el parlamento una proposición no de ley relativa a la constitución de una ponencia para dar respuesta a los problemas de la juventud y se aprobó una enmienda transaccional firmada por eh bildu y por el partido nacionalista vasco que instaba a seguir trabajando con el tercero plan joven y a la realización de la ponencia

se realizaron setenta y seis solicitudes de comparecencias y a la vista del gran número este se redujo a diecisiete en base a las prioridades de los partidos sin embargo para el plan joven no existe una partida presupuestaria específica y eso en un año

en el artículo diez del estatuto de gernika se detallan las materias en las que la comunidad autónoma del país vasco

y en el apartado treinta y nueve de dicho artículo dice así desarrollo comunitario condición femenina política infantil juvenil y de la tercera edad

el real decreto tres mil sesenta y nueve barra mil novecientos ochenta de veintiocho de septiembre

a la comunidad autónoma vasca señala que esta asume todas las competencias que hasta la fecha estaban atribuidas a la dirección general de juventud y promoción socio cultural

se dispone de un compendio de normas y documentos de referencia en materia de juventud que recogen ya una trayectoria y experiencia acumulada que resultó sin duda imprescindible para la ponencia y al finalizar esta ponencia publicados ya los resultados en el boletín el veintinueve de julio de dos mil dieciséis

la ley vasca de juventud y cito textualmente lo que decía

a elaborar la ley vasca de juventud de forma conjunta entre los diferentes departamentos del gobierno que desarrollan o deben desarrollar políticas que afecten a este colectivo

pero sin embargo no se ha hecho nada por cumplir con el mandato

y por eso desde elkarrekin podemos insistimos creemos que es de vital importancia para el colectivo joven la elaboración de una ley vasca de juventud una ley

y que tenga en cuenta las recomendaciones extraídas de la ponencia realizada durante estos últimos años y además en línea con lo que decía el señor redondo

o a veces no sé si decir la no situación laboral de la juventud está marcada por la alta precariedad la menor tasa de actividad y la mayor tasa de desempleo junto a una desconexión entre la formación adquirida y la cualificación de los puestos

creemos conveniente como así lo hacen ya los colectivos y también el mismo señor redondo que se garantice el acceso al empleo digno y de calidad para la juventud y así nos parecía que debíamos de poner énfasis y prestar atención a los siguientes temas de las recomendaciones de la ponencia de manera directa o indirecta el primero es el apoyo a los jóvenes que apuesten por un proyecto vinculado al medio rural

y la tercera pero no por ello menos importante es el apoyo al fomento de los contratos que compatibilicen la jornada laboral y el estudio con el fin de garantizar

pero además no hay que olvidar que la precarización de la juventud y su falta de oportunidades va más allá del empleo la falta de oportunidades de la juventud en ocios saludables la falta de una visión de la justicia juvenil como algo que vaya más allá de la delincuencia

en fin que ser joven es tener una complejidad de factores multidimensionales que no solo

sino que entorpecen nuestra capacidad de desarrollar vidas plenas en el momento que elijamos nosotros y nosotras creemos que eso tiene que cambiar y que ha de empezar por regular algunas cuestiones

y paso corto abordemos la ley de juventud aprovechando lo realizado hasta el momento los instrumentos

referencial que nos permita dar a nuestras personas jóvenes un futuro por el que merezca la pena luchar un futuro en que merezca la pena quedarse y que

y de mirar más allá de este porque no podemos olvidarnos de que al fin y al cabo un pueblo que no protege a sus jóvenes es un pueblo sin futuro

sigue teniendo una tasa de paro superior a la media europea uno de cada tres jóvenes menores de treinta años ninguna experiencia laboral uno de cada diez jóvenes vascos ha tenido ya una experiencia laboral en el extranjero uno de cada diez jóvenes con empleo es pluriempleado la temporalidad en el empleo juvenil supera con creces la media europea

con empleo trabaja por su cuenta se ha producido un notable incremento del trabajo parcial entre las mujeres

de quienes trabajan a tiempo parcial lo hacen por causas involuntarias solo la mitad de las y los jóvenes ocupados afirman tener un trabajo relacionado con su formación el salario medio de la juventud vasca es de mil euros un tercio de la juventud ocupada menor de treinta años riesgo de pérdida o precarización de su empleo más de un tercio de la juventud ocupada quiere cambiar de empleo tres de cada diez están buscando empleo aumenta el porcentaje de quienes llevan parados más de un año entre los jóvenes en desempleo solo uno de cada diez jóvenes desempleados se está planteando el autoempleo más de la mitad de la juventud está dispuesta a cambiar o rebajar sus expectativas laborales

se iría al extranjero si le ofrecieran un trabajo interesante esta es la realidad este es el análisis aquí no caben vaguedades aquí caben concreciones hau da

es la que diagnostica a través de esta radiografía cuál es la situación actual del empleo juvenil en euskadi cuáles son sus condiciones actuales

no podemos ser en absoluto conformistas ante cualquier dato positivo que se atisbe teniendo un porcentaje de paro tan superior al de la media europea

de forma incesante para garantizar una estabilidad en el empleo que a día de hoy es poco menos que una quimera para más de la mitad de los jóvenes con empleo tenemos que realizar una apuesta decidida por el emprendizaje

entre los jóvenes poniendo en práctica medidas efectivas que incentiven la puesta en marcha de nuevos proyectos que favorezcan el autoempleo y permitan poner en práctica la formación adquirida a través de nuevas empresas que innoven y renueven también el mercado productivo no podemos perder ni un solo segundo

desde todas las ópticas pero especialmente acabando con la temporalidad reduciendo los trabajos a tiempo parcial mejorando las condiciones de trabajo y también los salarios no podemos permitir que la brecha siga creciendo que la desigualdad forme parte del paisaje laboral

hasta que no tengamos una sociedad en igualdad en todos los aspectos también por supuesto en este hay que potenciar por tanto la puesta en marcha de los programas de formación dual y hay que hacerlo con un doble objetivo por un lado adecuar la formación a la oferta de empleo y dotar a los jóvenes de una salida laboral inmediata al término de su formación evitando así que nuestros jóvenes terminen en empleos que nada tienen que ver con la formación adquirida hay que reforzar las inspecciones de trabajo haciendo especial hincapié

evitando la cronificación en la condición de becarios y becarias garantizando también unas condiciones de trabajo dignas y un sueldo acorde a sus funciones

como medio económico de vida ni el conformismo ni la resignación ni mucho menos la sumisión entre los jóvenes deben de tener cabida en esta cuestión

además de masa crítica en esta sociedad un elemento fundamental protagonista

y el trabajo conjunto con las asociaciones y representantes de nuestra juventud en el desarrollo y puesta en marcha del plan de empleo juvenil que proponemos en el primer

y que también está incorporado en el programa de gobierno entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco los socialistas tenemos el firme convencimiento

ese plan de empleo específico para los jóvenes y lo vamos a hacer de acuerdo a sus necesidades y conforme debe hacerse frente a esa radiografía que exponía al inicio

un plan de empleo que ponga en marcha programas de formación dual con un claro compromiso de contratación que ponga en marcha un sistema de becas de transición del mundo educativo al mundo laboral que aplique programas de retorno juvenil y retenga el talento joven que facilite y fomente la cultura emprendedora en definitiva que aborde todas las alternativas posibles y sea efectivo en la puesta en marcha de medidas que palien las deficiencias del mercado laboral en lo que a nuestra juventud se refiere

y no nos podemos confundir en este punto no podemos fiar todo esto a una ley de juventud cuya tramitación ni tan siquiera se ha iniciado y que sin duda alguna nos llevará un tiempo que precisamente no es el mejor aliado para dar respuesta a todos estos problemas y a todas estas necesidades que tiene la juventud vasca

a nivel general ni tampoco debemos ser tan incautos de pensar que una ley de juventud per se

que sus problemas en este caso los problemas concretos de la juventud vasca en cuanto al empleo se refiere vayan a poderse canalizar o vayan a poder resolverse por el mero hecho de que vayamos a aprobar una ley de juventud no va a ser la ley de juventud ni el mantra ni la solución única y absoluta

si no ponemos planes en marcha acciones que implementen que den realismo y efectividad a los propósitos de esa legalidad que como repito de momento

cuando nosotros los socialistas vascos poníamos encima de la mesa la necesidad de aprobar una ley de juventud y que no lo hicimos

ostentábamos la responsabilidad de gobierno en el gobierno

y ustedes ustedes y ustedes y ustedes también se negaron hoy los socialistas vascos nos vamos a abstener y lo vamos a hacer precisamente por este motivo porque entendemos que la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil requiere de una urgencia que no es posible

de una ley de juventud y que dicho sea de paso siempre y no como otros nosotros lo hemos defendido lo defendíamos ayer lo defendemos hoy y lo seguiremos defendiendo

si por nosotros hubiera sido señorías hace más de siete años que los jóvenes vascos hubieran tenido una ley que garantizaría sus derechos

no es precisamente por nuestra culpa sino por la de aquellos que en varios momentos hasta en tres ocasiones se negaron a ello por tanto

bienvenidos a esta realidad desde luego que si hay que redactar una ley de juventud en los socialistas vascos tendrán unos colaboradores porque nosotros creemos en ello
y ya era hora de que una vez por todas ustedes se cayeran del guindo muchas gracias eskerrik asko andueza jauna

que la aprobación de una reforma laboral totalmente unilateral aprobada mediante un decreto de ley sin tener en cuenta ni a agentes sociales ni iniciar diálogos

no ha mejorado la situación del empleo y podríamos decir incluso que la ha empeorado

para reconocer la posibilidad de un marco laboral propio en euskadi y se materializase el traspaso de competencias que continuamos que se efectúe y como señalamos sigue pendiente desde el estatuto de gernika

señor bollain cuando usted nos trajo esta iniciativa yo acababa de aterrizar en la cámara y me la encontré y me la asignaron reconozco

y después de haber oído al lehendakari que fijaba sus objetivos precisamente para toda la legislatura el principal en las políticas de empleo

hacia los jóvenes es cierto que el panorama como usted describe en su exposición de motivos es demoledor es demoledor

del partido nacionalista vasca en estos momentos las cosas están mejor

en el dos mil once hemos evolucionado muy positivamente en esa tasa de desempleo aunque jóvenes podamos entender entre los catorce y los treinta a la hora de medir el desempleo juvenil

los que están entre los dieciocho y los veinticinco años y esa tasa está evolucionando positivamente claro el punto de partida era absolutamente

uno de cada dos con los estertores de la crisis en el dos mil doce subió por encima de la mitad hasta el cincuenta y cinco por ciento y ahora ya ha bajado en la media del estado

jóvenes en ese momento en dos mil once que querían trabajar y no podían trescientos sesenta y siete mil de los que se encuentran en esa edad lógicamente no son los mismos porque han pasado seis años y han salido ya de ese marco de edad

gracias entiendo a las medidas que desde diferentes instituciones se han llevado a cabo fundamentalmente por mucho que alguno no les guste y que se haya criticado

gracias en parte a la reforma laboral uno de cada tres o más de uno de cada tres de esos desempleados hoy cuentan ya con un empleo empleo que habrá que mejorar con el tiempo en condiciones y sobre todo respecto a la temporalidad de esos contratos pero la situación está mejorando en euskadi el punto de partida era muchos mejor si en el dos mil once había un cuarenta y ocho por ciento de tasa de desempleo de esos mejores aquí exclusivamente era un treinta y siete horrible

y va mejorando aunque sí es cierto que ya la tasa de desempleo el marginal está aumentando respecto del estado las cosas están evolucionando de otra manera tenemos mejor situación pero en movimiento es mucho más lento como ya se ha debatido por múltiples razones y en otras ocasiones desde esta

mejorar la formación dual mejorar las ayudas al autoempleo son cuestiones que insisto estaban en todos los programas políticos y por eso yo la auguraba muy poco recorrido porque llegaban usted presentó la iniciativa en diciembre llegaban las comparecencias de todos los consejeros después de que ya nos había marcado las líneas del gobierno el lehendakari y el calendario legislativo y pensábamos que esto iba a estar

y muy recogido en esas propuestas de gobierno y parece que no lo está tanto yo no voy a decir ni muchísimo menos que no preocupe al gobierno el empleo

su máxima prioridad en este momento y que las políticas de juventud

de la consejera exclusivamente porque es que esto va desde la formación desde la vivienda desde el departamento de cultura desde el propio de empleo lógicamente desde muchos sitios y desde luego

al emprendizaje pero entendíamos que era insuficiente ya bildu el grupo eh bildu apuntó en su moción a que lo que había que hacer era retomar los trabajos que se habían hecho en la ponencia de juventud de la pasada legislatura e instar al gobierno a que nos trajera un proyecto de ley oh sorpresa cuando a finales de febrero nos presentan su calendario legislativo

no está encima de la mesa sí es cierto que si estamos hablando de un elevado índice de desempleo un proyecto de ley de juventud no es la solución inmediata

por eso cuando vi la enmienda que presentaban desde los grupos que apoyan al gobierno tanto el partido nacionalista vasco

el plan de empleo es un instrumento más inmediato y más efectivo a corto plazo pero eso no quiere decir que no tengamos que dejar un marco

y otras políticas que la juventud está reclamando y está necesitando once de las diecisiete comunidades autónomas tienen aprobado ya un proyecto de ley es una competencia nuestra nos lo permite el estatuto y la constitución y por lo tanto tenemos que desarrollarla llevamos mucho tiempo y ha habido intentos

el señor andueza dice que es culpa de todos los grupos de la cámara que lo tumbaron

que no ha gustado a ningún grupo que no ha sido consensuado con ningún grupo

ese proyecto de ley sale adelante es como si en cumplimiento del calendario legislativo nos vuelven a traer un nuevo estatuto del empleado público vasco

con las fuerzas sindicales que representan a todos los trabajadores del sector público sería culpa de la cámara tumbarlo hombre no

un proyecto de ley de su enmienda me ha llamado mucho la atención

a que haga planes a que cumpla a que haga la formación dual a que tenemos también que ayudar al emprendizaje si ustedes sustentan al gobierno acaso no confían en las políticas que ya están puestas en marcha es decir los planes estratégicos del gobierno ya están presentados y se están llevando a cabo en estos momentos los presupuestos están encima de la mesa

tenemos que volver a instar al gobierno para que haga algo que se supone que ya

pues yo creo que no es suficiente confiemos en que efectivamente esos presupuestos que entre otros grupos vamos a colaborar en mejorar pues habrá que aumentar partidas

para el emprendizaje para el apoyo del autoempleo de esos jóvenes no olvidemos que una salida de trabajo fundamental para los jóvenes para los menores de treinta años es

y la creación de su propia empresa que al fin y al cabo es el modelo que ha funcionado en este país durante muchos años y que los autónomos y las pequeñas empresas son el motor de nuestra economía y no debemos dejarlo de lado y por eso desde los presupuestos de la comunidad debe apoyarse por eso nosotros

por la enmienda del acuerdo enmienda que han llegado entre podemos y bildu que nosotros hemos matizado y que estamos de acuerdo con él para instar al gobierno a que efectivamente cumpla las peticiones de esa ponencia larga ponencia que duró tres años a iniciativa del partido socialista y que finalizó

que se haga una ley de juventud insisto no es el mejor instrumento en este momento para políticas cortas para

de mejorarlos y trataremos de tender en todo momento la mano al gobierno para colaborar en esas políticas que saquen del desempleo a nuestros jóvenes a la que dicen que es la juventud mejor formada de la historia pero que no tiene posibilidades de demostrarlo por eso no quiero decir que la

pero damos por hecho que ese instar al gobierno una de dos o nos vamos a la película de algunos hombres buenos de por qué hay que repetir cincuenta veces lo mismo qué es porque no nos va a escuchar el gobierno o

que los concentre mejor en todo lo que es relativo

a que efectivamente en un plazo aceptable que puede ser dentro de este año dos mil diecisiete se nos plantee un proyecto de ley completo

a todas y cada una de las peticiones que ya se recogieron en esa ponencia aprobada
en junio del dos mil dieciséis muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos bollain jauna

al principio de su intervención no puedo

incomprensible para mí que el partido socialista de euskadi haya transaccionado

a esa enmienda con sus socios de gobierno yo creo que esto demuestra en parte un poquito hasta qué punto tienen ustedes las manos

la proposición no de ley en relación con la ley vasca de juventud

una ley de juventud sería el marco operativo en el que articular las políticas integrales destinadas a las personas jóvenes dentro del marco competencial de la comunidad autónoma del país vasco y sinceramente pues me da pena vuestra

a la creación de esta ley vasca de juventud y

en lo que decían allá por el dos mil trece y por eso creo que

ustedes mismos estaban exigiendo porque

el partido nacionalista vasco va radicalmente en contra de lo que afirmaban ustedes cuando decían que desde el punto de vista normativo la comunidad autónoma de euskadi

de referencia en materia de juventud que es imprescindible aprovechar pero sigue resultando insuficiente para garantizar una política integral de juventud

hace cuatro años lo dicen hoy también igual pero qué pasa que lo que en dos mil trece era insuficiente hoy en día es más que suficiente no lo sé y señor ruiz de arbulo bueno dentro de mi

en la política creo que en política lo más importante para trabajar por la ciudadanía en este caso por la juventud

y cómo no sobre todo saber reconocer nuestros errores y por eso hemos creído conveniente para llegar a buen puerto ser flexibles

lo que desde todos los ámbitos se nos ha pedido con una negociación la verdad bastante fácil porque con buena voluntad todo es posible

que habéis trabajado para que esta enmienda transaccional quedase lo más completa posible

de juventud no son ni deben estar jamás reñidos con una ley integral de juventud vasca porque al fin y acabo lo que ustedes están haciendo con vuestra enmienda que

es coger la ponencia y recortarla a su manera

toda la ponencia pero quitamos el primer punto que es el más importante quitamos el primer punto de las recomendaciones de la misma ya que no nos interesa verdad

ser consecuentes con lo que se propone y si queremos tomar como referencia la ponencia realizada no podemos obviar el punto número uno

el punto número uno el cual empieza se insta al gobierno vasco a elaborar la ley vasca de juventud y así una vez más bueno me alegro enormemente de que esta enmienda transaccionada vaya a salir adelante

que la juventud solo sea el futuro sino he dicho que un pueblo que no protege a su juventud es un pueblo sin futuro y también lo decía el mismo

que a mí me gusta mucho decía que debemos ver a la juventud no como botellas vacías que hay que llenar sino como velas que hay que encender

para no dirigirnos a un futuro negro sino a uno radiante
y que brille en sí mismo eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

zurea da hitza me preocupa pensar que puedo estar envejeciendo de mala manera no quisiera

ni tan siquiera en su iniciativa ustedes venían a hablar de empleo juvenil y han terminado hablando de lo que otros llevamos reclamando más de siete años por tanto no venga usted aquí

reclamándola no tenga tanta cara está bien está muy bien que por fin

a reconocer el trabajo que otros llevamos haciendo muchos años está perfecto en cualquier caso espero que ustedes no sean tan incautos de pensar que a través de esa ley de juventud en un plazo breve de tiempo el problema de empleo de la juventud vasca vaya a solucionarse porque entre otras cosas esa tramitación nos puede llevar más o menos dos años

a que la ley de juventud vaya a tramitarse y vaya a aprobarse en un plazo breve de tiempo teniendo el conocimiento que tienen me parece poco menos que una frivolidad y un acto de hipocresía sigo con usted señor bollain ustedes

un plan de empleo en su transacción por tanto qué debe hacer el gobierno se debe centrar única y exclusivamente en aprobar una ley de juventud dejando de lado algo que supuestamente ustedes defendían en su iniciativa de origen pues lo podemos hacer pero muy probablemente los jóvenes vascos no verán solucionados sus problemas si eso lo fiamos a que tengamos una ley de juventud vaya usted a saber si dentro de dos años teniendo en cuenta

quizá con los que ahora son sus socios en esta cuestión el partido popular ustedes decían

nosotros no tenemos las manos atadas nosotros lo que tenemos es un sentido de la lealtad que probablemente ustedes no tengan

de una ley de juventud que no tendremos ningún tipo de complejo ni en defender ni en trabajar

al gobierno porque cuando se negocia hay cosas que se deben de dejar en la gatera y nosotros vamos a ser leales al gobierno de la misma manera que seremos leales a nuestros principios cuando esa ley de juventud venga a este parlamento pero hombre que usted me diga a mí

las manos atadas cuando ustedes repito y reitero ni habían mencionado la ley de juventud y se han visto fagocitados por bildu que era el que realmente la pedía en fin mírense ustedes al espejo antes de hablar de lo que nos pasa a los demás mírense al espejo

porque en fin cuando quieren son todo uno y cuando quieren son cuatro partidos y le recuerdo que hace siete años ea

cuando el partido socialista trajo aquí un proyecto de ley de juventud qué pasa que las condiciones de los jóvenes vascos han cambiado tanto en siete años porque ustedes hace tres años también se negaron cuando los socialistas vascos trajimos a esta cámara la solicitud o el impulso a una ley de juventud ustedes votaron en contra no me diga que no

no se obcequen qué pasa que las condiciones han cambiado tanto en siete años nosotros reconocemos que una ley de juventud no es la herramienta

encima de la mesa por no poner no han hecho ni un diagnóstico serio con datos tangible y objetivo de cuál es la propia situación lo hemos hecho nosotros

pero en fin cosas que pasan señor arbulo es curioso que usted

el hecho de que tengamos más empleo con el que tengamos mejor empleo puede haber más empleo pero hay más precariedad hay más

lópez de ocariz y voy terminando señora presidenta si tanto a ustedes les preocupa esta cuestión podrían habérselo trabajado un poquito y haber presentado una enmienda a través de la cual

sus aportaciones pero como siempre prefieren ustedes permanecer en el letargo para venir después

a soltar viajes sin ningún fundamento y sabe por qué le digo lo de sin ningún fundamento porque ustedes

de haber traído un proyecto de ley a este parlamento primero sin participación y segundo sin consenso primero le voy a decir una cosa

después de haber realizado un proceso participativo y segundo no solo eso

con un dictamen aprobado que se trajo a este pleno y que ustedes a última hora votaron en contra

ustedes votaron en contra por tanto cuando realice acusaciones por favor

me generó sorpresa la iniciativa

muy poco recorrido porque confiaba más en lo que nos iba a traer en su calendario legislativo el gobierno

efectivamente de que la planteara para que hoy el parlamento pueda volver a instar al gobierno a que ponga en marcha esa ley de juventud insisto paralela a todos los planes que ya están en marcha y en los nuevos que está elaborando el ejecutivo y al que tendemos la mano para

uno de cada tres vascos que querían trabajar entre los dieciocho y veinticinco años

no pueden encontrar trabajo ni aquí ni en ningún sitio por eso creo que efectivamente cualquier iniciativa es buena unos planes de empleo a corto plazo y una ley

no solamente del empleo porque es que sin empleo los jóvenes no pueden desarrollar su actividad vital no pueden tener las opciones que todos queremos que tengan precisamente pero por eso

es tener empleo empleo a secas que será mejorable en el tiempo señor andueza usted y yo o su grupo y nuestro grupo tienen

diferentes de lo que es el empleo de lo que hay que generar y de cómo hay que generarlo pero yo le pongo los números encima de la mesa cuando ustedes dejaron de gobernar

entre los dieciocho y los veinticinco años no podían trabajar hoy

ya no lo son han encontrado un empleo usted por lo que nos ha dicho aquí el desastre de la reforma laboral el desastre de las medidas tomadas por el gobierno y esos empleos son horrorosos ya veo que usted prefiere que siguiera

parados como en otras comunidades autónomas donde han seguido gobernando desde dos mil once hasta ahora nosotros preferimos que esos jóvenes

y las medidas que se han tomado están encima de la mesa y los datos de empleo que están bajando mes a mes trimestre a trimestre son positivos hay mucho trabajo por hacer

para finalizar señora etxebarrieta no sé por qué pone usted en duda que yo sea joven sinceramente no sé en qué dato se ha basado usted para dejarnos al señor andueza y a mi fuera de ese debate de los jóvenes como si no tuviéramos interés ya me explicará usted en qué se ha basado me ha dejado

en esta ley es que yo tengo dos hijos que han entrado ya en ese periodo al que la ponencia hacía referencia esos jóvenes esos chavales de los catorce y los treinta años luego yo soy uno de los primeros preocupados en esta cámara por el futuro no solamente de mis hijos
sino el de toda la gente de su edad muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

en relación con una cuestión que no es nueva en esta cámara

y es el seguir estableciendo medidas cauces de actuación de fomento de desarrollo de aportación de análisis de reflexión en relación con unas fórmulas económicas y sociales que son las que forman parte de la economía social

este parlamento quiere y pretende seguir enmarcando la situación y seguir desarrollando fomentando la economía social a través de en primer lugar

con la materia como lo hemos hecho en legislaturas anteriores tenemos que recordar las interesantes experiencias en relación con la economía social que ha vivido este parlamento la legislatura octavo aparte de haberse aprobado sociedad cooperativa pequeña también se encargó por el parlamento al gobierno una comunicación en relación con la economía social a partir de unos acuerdos que el gobierno y el consejo superior de cooperativas konfekoop

y ese debate se tuvo en la cámara debatimos sobre economía social se aportaron propuestas de resolución lo mismo que en la legislatura

de marzo del dos mil once también la comisión

con la economía social y de esas propuestas de resolución tenemos que decir que fueron debates constructivos porque lo fundamental de esos debates fue la generación de ámbitos de acuerdo y de entendimiento y de propuestas de resolución la mayoría de ellas aprobadas

cuestiones tan importantes como aparte de las medidas de fomento la creación de un observatorio sobre la economía social observatorio al que luego me referiré que todos los años establece una serie de informes una serie de análisis y que en este caso

y para conocer la situación en la legislatura pasada

porque yo creo que es bueno encargar este tipo de análisis y de planes

la situación y hubo una comunicación en este caso no hubo un debate

esa comunicación que nos sirvió como referencia traerla aquí conocer la situación a lo largo de este año y debatirla

los grupos parlamentarios aportar como lo hemos hecho

establezca las comunicaciones lo normal es que se debatan

pero lo bueno es que la tengamos y que trabajemos eso sí ponemos fecha el año

como fecha para la elaboración la confección de esa comunicación o sea que damos tiempo al gobierno alguien puede pensar que es demasiado tiempo bueno nos ha parecido bien

y abordar ese debate el gobierno tiene que hacer muchas más cosas en relación con la economía social tiene pendiente también la ley de cooperativas la reforma tendrá pendiente también

pero en cualquier caso está bien durante estos años también ha habido

se aprobó por unanimidad en el congreso de los diputados una ley de economía social que definía la economía social que hablaba de la creación

en españa que daba también deberes a las comunidades autónomas que permitía a las comunidades autónomas seguir incidiendo en el desarrollo en el análisis en el fomento de la economía social

comunidades autónomas efectivamente han cogido el guante como galicia e hicieron el año pasado antes hemos estado hablando

a ver primero el análisis de la comunicación pero comunidades como galicia que van a la vanguardia de la generación y sobre todo en esta última legislatura de la producción normativa crearon hicieron y aprobaron una ley de economía social importante también y que

el sector de la economía social en galicia se lo agradeció nosotros lo que queremos qué pretendemos con este acuerdo seguir madurando seguir

qué porque la economía social resiste mejor que el conjunto de la economía en estos momentos de crisis y de salida de la crisis

ahí están los informes del observatorio vasco de la economía social en ese reciente informe en relación con los últimos cuatro años es un informe que presentaron en diciembre de dos mil dieciséis y que habla de los años

y ha demostrado con datos que la economía social resiste mejor es generadora de producción de innovación y es generadora de puestos de trabajo yo creo que ese es el elemento fundamental

pueden analizar vuelvo a decir ese informe

que aborda los últimos años hecho por el observatorio vasco de la economía social en diciembre de dos mil dieciséis que yo aconsejo también a quienes no lo conocen que lo lean porque

se desconoce o no se entiende muy bien todos tenemos que decir que las cooperativas

de inserción los centros especiales de empleo las mutualidades las cofradías de pescadores asociaciones y fundaciones con actividad económica pues bueno todo eso es un tejido económico que está ahí y que desde luego tenemos que seguir potenciando y tenemos que seguir desarrollando y nosotros

el llegar a un máximo acuerdo en relación con esta cuestión que yo creo que los grupos

aceptarán de alguna manera porque yo creo que es importante es interesante como lo fue

utilizarlo y servirlo incluso debatirlo y aportar por recordar la última comunicación

vino el treinta de septiembre de dos mil catorce

efectivamente hablando de estas cuestiones la anterior fue del dos mil once en la anterior legislatura y la anterior fue del dos mil ocho y hemos hablado del objeto

de la economía social hemos hablado de los antecedentes porque hay muchas

rodean al fenómeno de la economía social no solamente circunstancias locales o de que hay más cooperativas o de que hay más empleo en las cooperativas sino circunstancias de informes de la unión europea de informes internacionales o de informes mundiales

por el papel de la persona en la actividad económica la economía social eso es el papel de la persona más que el papel puramente del agente económico bueno son elementos importantes que rodean

en el parlamento europeo los pasos adelante de la comisión y del consejo en relación con declaraciones importantes del fomento de la economía social la economía social tiene expresiones muy distintas en europa tienen muy distinta la economía de euskadi

yo creo que lo analizarán y lo analizaremos bien también

se hablaba de europa también de todos esos antecedentes también se describía la situación en dos mil catorce en un momento de salida de la crisis pero también todavía de incidencia

la economía social iba resistiendo mejor que el conjunto de la economía en relación con los sectores

porque cada día hay más fórmulas y más modalidades que se integran dentro del papel de la economía social y que entroncan con el tercer sector con la economía solidaria bueno con fórmulas económicas que desde luego

y con el fomento en definitiva en esa comunicación fomento medidas cuestiones de impulso a las que se comprometía el gobierno veremos también tenemos una serie de iniciativas parlamentarias en relación con esa comunicación para saber

que se planteaban en dos mil catorce se han ido consiguiendo

ese planteamiento nuevo ese informe de situación nuevo y ese debate que yo creo que va a ser importante además en la antesala de la nueva ley de cooperativas que se presentará yo creo

ideas al gobierno yo está claro que la satisfacción es haber llegado a un acuerdo

el parlamento vasco es conocedor de la relevancia que tiene la economía social

y se reafirma en su compromiso de seguir trabajando en su conocimiento desarrollo y progreso

la siguiente pero que también es el parlamento vasco otras instituciones tienen mucho que decir en relación con el fomento y el desarrollo de la economía social no digamos nada las juntas generales o las diputaciones en relación a las cuestiones que afectan a su situación fiscal financiera

que tienen que favorecer esa forma de producción económica que es la economía social pero bueno en cualquier caso la propia comunicación de gobierno y el propio

pueden indicar pueden instar a otras instituciones

eso ha pasado ya en las anteriores debates de las comunicaciones del gobierno el segundo punto es

a que realice antes de finalizar este año una comunicación que analice y valore la situación

sus nuevas necesidades y retos e informe sobre las iniciativas medidas y actividades de fomento impulso para que las empresas de la economía social puedan incrementar su papel en la generación de empleo

fundamental de la comunicación cosas conocer cómo estamos conocer cómo hemos

y conocer y saber y proponer y ver qué podemos hacer en relación con una fórmula económica vuelvo a decir la economía social que ha resistido mucho mejor

que el conjunto de la economía en general o sea que en ese sentido tenemos un campo en el que trabajar

un campo el de la economía social que entronca perfectamente con lo que hemos hablado antes con el papel de la juventud en relación con las junior cooperativas en relación con las sociedades cooperativas pequeñas que permiten al nuevo graduado al nuevo titulado en las diferentes formaciones profesionales o universitarias o académicas

con más facilidad o con más posibilidades de éxito que la

están más anquilosadas en relación con esa cuestión o sea que en ese sentido estamos en el camino

es una fórmula que funciona que entronca con las necesidades

los trabajadores con el nuevo empleo y con la juventud y para finalizar sí que décimos que la citada comunicación será presentada por el gobierno vasco analizada y debatida en la comisión de trabajo y justicia en el primer trimestre de dos mil dieciocho es normal recibiremos la comunicación

y la debatiremos yo creo que de una manera clara y de una manera positiva

behatzen dugu eta zuzendaritza horretan y en esa dirección que se ocupa del desarrollo legislativo de las sociedades cooperativas

de las sociedades anónimas y limitadas laborales nos dice que y cito textualmente la consolidación de un sector empresarial competitivo y sostenible debe ser

por la creación de empresas de economía social difundiendo sus valores y principios y ampliando el reconocimiento a las entidades de la economía solidaria las entidades que desarrollan los centros especiales de empleo y a las agrupaciones

autónomos esto es lo que nos dice la dirección del departamento de trabajo y justicia beste alde batetik espainiar

nos dice primacía de las personas y del fin social sobre el capital que se concreta en una gestión autónoma y transparente

y participativa que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios que en relación a sus aportaciones al capital social ese es uno de los principios segundo principio aplicación de los resultados obtenidos a la actividad

promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local la igualdad de oportunidades

la inserción de personas en riesgo de exclusión social la generación de empleo estable y de calidad la conciliación de la vida personal familiar y laboral y la sostenibilidad

independencia respecto a los poderes públicos estos son los cuatro principios

empresarial española respecto a la economía social también quería hacer una referencia a la carta de la economía solidaria

la economía solidaria como un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas

como referencia prioritaria por encima de otros intereses por lo tanto la economía social y solidaria en sus formas más diversas es una manera de vivir que abarca la integralidad de las personas y designa

de la economía a su verdadera finalidad proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo humano personal

la importancia que desde este grupo parlamentario le damos a todas estas definiciones marca la diferencia esencial a nuestro juicio

creemos que debe jugar la economía social puesto que aun siendo muy importante la creación y el fomento del empleo desde nuestro punto de vista la empresa de economía social es un claro ejemplo

y el progreso social son compatibles de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social de cómo otra forma de hacer empresa es posible y es por eso por lo que nuestro grupo propone que la comunicación que presente el gobierno

en la comisión parlamentaria de desarrollo económico porque señoras y señores parlamentarias

que nuestro país necesita un nuevo modelo de empresas empresas que pongan en práctica políticas empresariales modelos y herramientas de gestión basados en los principios que acabo de mencionar un modelo que haga posible el desarrollo humano de todos sus miembros que regule la participación de las personas trabajadoras tanto en la gestión y en el capital como la distribución de los resultados para nosotras la economía social no es simplemente un sector marginal que puede ser

que puede servir coyunturalmente para crear unos cuantos empleos sino que puede ser la oportunidad para ayudar a superar

en cuya presentación en el departamento de desarrollo económico en su presentación

y cito textualmente su misión es liderar ámbitos que inciden de manera directa en la economía productiva de euskadi y que busca contribuir a superar la crisis económica apostando

adecuada a nuestras capacidades y a medida de las necesidades y aspiraciones de la sociedad vasca en definitiva la economía social no debe ser tomada simplemente como un modelo marginal sino como un modelo humanista

que promueve el empleo sí pero un empleo de calidad y una gestión compartida para un mayor equilibrio en la distribución de la riqueza

y lo voy a repetir porque para nosotras es imprescindible en un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable como referencia prioritaria por encima de otros muchos interés en este enfoque confluyen

innovación agricultura pesca

es decir ámbitos que inciden de manera directa en la economía productiva de euskadi pero también una gestión autónoma y transparente democrática y participativa el desarrollo local

la cohesión social la inserción de personas en riesgo de exclusión social la generación de empleo estable y de calidad

de la vida personal familiar y laboral y la sostenibilidad al igual que la economía de los cuidados todo esto responde

todos los sectores productivos y reproductivos para permitir un desarrollo que conjugue la colaboración interna con una

para crear empleo y bienestar eso sí optimizando los recursos del planeta por eso desde nuestro grupo pensamos que es

se remita desde el gobierno esta comunicación sobre la economía social y que sea debatida como acabo de decir en la comisión
de desarrollo económico y no en la comisión de trabajo mila esker eskerrik asko zabala

eta hori ez da kasualitatea la propuesta que hoy pone sobre la mesa el señor barrio consideramos que podría ser un buen punto de arranque para esta legislatura

en esta legislatura en la que como ya se ha dicho el gobierno prevé traer por ejemplo la nueva ley de cooperativas

creemos que es importante al igual que se hizo en anteriores legislaturas

pero también creemos que este informe debería de tener y es fundamental que se elabore junto con los propios agentes de la economía social porque quién mejor que los propios agentes de la economía social para saber cuáles son sus retos y cuáles son las necesidades que tienen

debería de ir mucho más allá de enumerar las iniciativas y actividades de fomento de la economía social porque debería de contemplar los compromisos que adopta el gobierno

y dicha difusión porque de eso se trata de comprometernos de comprometernos todos y todas y especialmente el gobierno porque en la economía social hay mucho hombres y mujeres trabajando por un país mejor y más avanzado

y no solo en el ámbito productivo también en el ámbito educativo o en el cultural por ejemplo la economía social no es algo anecdótico es un agente activo y como tal debe de ser tratado en todos los ámbitos

hoy nos encontramos con una enmienda transada por los grupos que respaldan al gobierno y partido popular esa nueva relación que tenemos

nuestra intención era lograr el máximo acuerdo no ha hecho usted eso y lo sabe que no lo ha hecho y lo hemos hablado no lo ha hecho y lo tenía muy fácil

que es necesario traer una comunicación en relación a la economía social

han puesto unos matices nosotros hemos puesto que debía de contarse con los agentes de la economía social que el gobierno tenía que escribir los compromisos que iba a tomar en relación a la economía social pero la realidad es que solo han hablado los tres partidos

porque al parecer pues bueno esa manía de que no se puede firmar con euskal herria bildu que ya es hora de que empiecen a madurar

en política también más allá de los clichés que tanto les gusta mantener porque no es nuestro caso nosotras estamos dispuestas a hablar con todos los grupos parlamentarios

en esta proposición no de ley y creo que era una buena oportunidad

para haber podido conseguir un acuerdo de todos los grupos parlamentarios en relación

tan importante en el tejido económico de nuestro país como es la economía social

estamos hablando yo lo he dicho en el acuerdo que ustedes han firmado

ni rastro de contar con los agentes de la economía social no creo que sea nada raro decir que los agentes de la economía social participen

porque ellos son los que conocen su realidad ni rastro y ni rastro de que el gobierno vasco escriba deje negro sobre blanco los compromisos que debe adquirir y nosotros creemos que debe de adquirir

en relación a la economía social por lo tanto se ha perdido una gran oportunidad para que este parlamento tuviera una posición conjunta una posición unánime

porque los partidos que sustentan al gobierno y el partido popular han decidido que con su acuerdo era suficiente y que hasta ahí iban a leer y que por lo tanto

un acuerdo por lo tanto nuestro voto va a ser la abstención eskerrik asko pinedo andrea

muchas gracias presidenta señorías en este punto del orden

por parte del gobierno vasco de una comunicación sobre economía social la economía social el tercer sector de las economías situada entre el sector

en plena expansión en las dos últimas décadas

aunque no exenta de dificultades el tejido de la economía social de euskadi es un referente a nivel europeo y a nivel internacional

el gran valor que se ha dado desde su origen dentro del parlamento vasco a la economía social y que como no puede ser de otra manera debemos seguir

la economía social supone un paso importantísimo en la participación y democratización de la empresa dado que la doble condición de trabajador y empresario

una unidad de generación de riqueza que satisface a todos los que participan en ella el gobierno vasco apuesta por la economía social

las cooperativas las sociedades laborales y otras entidades con vocación social como pueden ser los centros especiales de empleo empresas de inserción

asociaciones de utilidad pública que promueven el interés general en ámbitos cívicos educativos científicos culturales deportivos y sanitarios así como

tal como puso de manifiesto la consejera de trabajo y justicia el treinta y uno de enero en su comparecencia para presentar el plan de legislatura ante la comisión de trabajo y justicia la economía social desarrolla la actividad

manufacturera el comercio y la educación en euskadi están registradas mil quinientos diecisiete cooperativas ochocientos cuarenta y seis sociedades laborales

empleos suponiendo el seis coma doce por ciento del total del empleo de la comunidad autónoma vasca

más relevancia tratando de generar un empleo de calidad

realizar medidas que adecúen la normativa reguladora entre ellas una de las necesidades existentes y que es una asignatura pendiente de la anterior legislatura está la elaboración de la ley de cooperativas la consejera de trabajo y justicia ya nos anunció

que es intención del departamento iniciar un recorrido participativo

cuyo texto esperan esté culminado para finales del dos mil diecisiete para su envío al parlamento en el primer semestre del dos mil dieciocho

ya la manifestó la propia consejera de trabajo y justicia

con las políticas territoriales de desarrollo local con presencia efectiva de la economía social en políticas transversales de emprendimiento así como de la necesidad de propiciar la ampliación de la base societaria y de todo tipo

facilitando herramientas de gestión empresarial y societaria a las empresas existentes y fortaleciendo las entidades asociativas hay que seguir dando pasos en esta línea

y que desarrollan un papel clave en el ámbito local en el acuerdo de gobierno entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista se señala la importancia de impulsar la creación de nuevas empresas de economía social y la consolidación

en todos los sectores económicos apoyando la constitución de consorcios y de redes de cooperación para reforzar la capacidad de actuación así como la necesidad de actuar transversalmente desde el gobierno para apoyar el sector en materia de innovación calidad

también de la necesidad de divulgar la formación e información de la economía social en todos los niveles y ámbitos educativos la consejera de trabajo y justicia ya puso de manifiesto que entre sus objetivos está

con las organizaciones representativas del sector y creo que esto es importante por eso hemos firmado esa enmienda transaccional entre el partido nacionalista vasco nosotros mismos los socialistas vascos y el partido

en la que se establece que el parlamento vasco conocedor de la relevancia que tiene la economía social en sus diferentes manifestaciones en nuestra comunidad autónoma vasca se reafirma en el compromiso de seguir trabajado en su conocimiento desarrollo y progreso

al gobierno vasco a que realice antes de finalizar este año una comunicación que analice y valore la situación de la economía social

y que identifique sus nuevas necesidades y retos e informe sobre las iniciativas medidas y actividades de fomento impulso difusión

económico la citada comunicación será presentada por el gobierno vasco analizada y debatida en la comisión de trabajo y justicia dice también esa enmienda

en el primer trimestre del dos mil dieciocho estamos completamente de acuerdo en que en estos momentos sería conveniente realizar esta comunicación otra comunicación al inicio de esta legislatura porque se han producido en los dos últimos años nuevas necesidades normativas

en cuenta y tomar como referencia ante las

y el nuevo papel del socio del trabajador de las empresas de la economía social que hace necesario la realización de la misma yo creo que esta enmienda transaccional no distaba mucho de las enmiendas también presentadas las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos eh bildu

elkarrekin podemos por parte de la señora pinedo y la señora

desde luego la iniciativa no era del grupo socialista era del grupo popular y a ellos les correspondía

grupo que ha presentado la misma el buscar consenso con más grupos parlamentarios yo creo que las diferencias eran

amplio dentro de una iniciativa yo creo que tiene gran

en el ámbito de la economía social no ha podido ser así pero les invito porque las diferencias son muy pocas a que voten a favor de la enmienda transaccional

gracias presidenta señora pinedo gracias por sus consejos y asumo la bronca que me ha echado también en relación con esta cuestión pero yo creo que al final

sobre lo que le hemos pedido al gobierno que nos traiga y en ese sentido

sumado perfectamente ya sé que adopta la posición de abstención

seguramente para protestar por esa estrategia o por esa posición que nosotros tenemos en relación como fórmula por nuestros acuerdos pero en cualquier caso yo creo que usted está básicamente de acuerdo con lo que hemos dicho porque todos

hemos hablado de lo mismo cuando estábamos hablando de la economía social fórmula que la economía social que ha resistido desarrollo

desarrollo sostenible empleo personas en el centro de la actividad económica en relación con su papel dentro de las diferentes modalidades o fórmulas

y todos hemos valorado los datos propios en relación con lo que hay

y señora pinedo no me cabe ninguna duda no me cabe ninguna duda porque es que no puede ser de otra manera

los agentes de la economía social no me cabe ninguna duda fíjese usted el primer debate de una comunicación del gobierno que solicitamos que mi grupo solicitó allá por dos mil ocho en relación con la economía social fue sobre una cuestión que habían acordado el gobierno vasco el consejo superior de cooperativas y la propia asociación de cooperativas

de euskadi en ese sentido ya se hizo juntamente con el sector

y además que ese acuerdo y esa comunicación sirvió para que el gobierno

también con las instituciones representativas de la sociedades laborales con asle en cualquier caso

con ese tipo de comunicaciones es precisamente la unión y el trabajo con los agentes de la economía social y no me cabe ninguna duda porque además lo necesita

se apoyará en los datos que le dan las entidades los sectores los agentes de la economía social no me cabe ninguna duda de que el gobierno

en la red eges que es la red vasca de entidades de economía social

se apoyará en lo que el instituto de deusto de derecho cooperativo dice y hace y trabaja y no me cabe ninguna duda que se apoyará en lo que

a pie de tierra no y no me cabe ninguna duda de que seguirá haciendo e informándose de lo que diga

las coordinadoras de los centros de inserción de los centros de empleo y de lo digan otras coordinadoras de otras fórmulas de economía social o sea que en ese sentido

no se ha nombrado esa circunstancia que usted proponía como esencial porque es que va de suyo va de suyo en una fórmula de informe de estas características no lo puede hacer el gobierno solo porque además se notaría o sea que el gobierno se tiene que implicar a la hora de buscar esas referencias

la comisión yo creo que la comisión el ubicar la comisión del debate

economía y de competitividad de desarrollo económico desarrollo económico no sé no importa tanto

y justicia porque el informe y la comunicación le va a encargar a la señora san josé y

eso no es lo esencial como lo esencial tampoco son que sean seis meses como dice usted nosotros proponemos nueve o sea que prácticamente es lo mismo o sea yo creo que podrían reflexionar la señora

un debate que seguramente será de acuerdos básicamente pero será de desarrollo

porque las iniciativas que salen de los debates anteriores o de las comunicaciones anteriores se proyectan

la inclusión de las cuentas satélites es decir la estrategia vasca de responsabilidad social empresarial bueno fomentar la responsabilidad social empresarial es decir hay un montón de cuestiones que se han ser agente activo interlocución y participación activa

que nosotros lo vamos a traer además a esta cámara nosotros tenemos dos proposiciones de ley que van a venir dentro de poco

en consideración y esperamos que definitivamente convertirse en ley para que las entidades de la economía social se integren en ámbitos donde no estaban por ejemplo en el consejo de educación de euskadi donde no estaban las cooperativas que son cerca del veinticuatro por ciento

de las cooperativas de enseñanza o en la spri en relación con la posibilidad

de los consejos o sea que estamos trabajando en la búsqueda de esa interlocución hay muchas otras cuestiones se me ha acabado el tiempo acabo señora presidenta pero yo creo que básicamente la señora zabala y la señora pinedo están absolutamente de acuerdo con lo que es la filosofía de la iniciativa y

el cauce que nos permita seguir hablando y seguir desarrollando la economía social porque vuelvo a decir el discurso de fondo curiosamente

bi mila bederatzian ayudas para la promoción de la economía social seis millónes

adierazi dut zelan heldu zareten akordio honetara y como decía ahora mismo una compañera mía si vamos a hablar de economía social y de los valores de la economía social y entre ellos la cooperación y el acuerdo

con esta enmienda de transacción ni cooperación ni acuerdo no porque lo primero que ha hecho ha sido vetar el hablar con dos grupos y eso se llama no predicar con el ejemplo señor barrio no se puede alabar un estilo y luego

otro muy distinto que es el que usted no decía el de la economía tradicional o el de la economía liberal que el otro día un compañero suyo alababa con tanta emoción y tantas ganas cuando yo decía que había que elaborar ese informe en colaboración con los agentes de la economía social

se apoyará en los diferentes informes de diferentes organizaciones y se informará

de lo que dice por ejemplo konfecoop y otras asociaciones de cooperativas eso no es colaborar señor barrio

eso no es colaborar eso es ir y leer lo que otro ha dicho eso no es colaborar colaborar es un trabajo conjunto un trabajo entre

eso no es colaborar eso es mirar desde el telescopio que es lo que habitualmente se suele hacer desde algunos ámbitos en este gobierno mirar desde el telescopio

e insisto compromisos del gobierno sí compromisos del gobierno respecto a la economía social sector por sector

porque otra vez estamos hablando de la economía social como la hermana fea de la economía

sí sí hablamos otra vez de la economía social como la hermana fea de la economía porque mientras agentes de la economía tradicional están presentes

pues parece que tiene que ser algo así como bonito que queda bien de vez en cuando hablar de los valores de la economía social pero luego nos olvidamos de ella cuando se trata de hablar de economía de desarrollo de un pueblo y de trabajar porque este pueblo siga adelante

una aportación fundamental al futuro de este país

a lo de siempre a trabajar no con sino con bueno sí te llamo a ver que me cuentas

ya me encargaré yo de escribir y eso es lo que viene y además si era tan fácil si como usted ha dicho en realidad no había mucho

en la enmienda transaccional que se elaborará este informe en colaboración

yo creo como ha dicho el señor

está claro que en el fondo todos en la iniciativa de hoy estamos de acuerdo con pequeños matices de diferencia yo creo que hubiera sido

conseguir un mayor consenso en este punto era muy sencillo yo creo pero al menos la enmienda transaccional cuenta con mayoría para ser aprobada hoy en esta cámara y eso por lo menos es lo importante para seguir avanzando

ya lo dijo la consejera de trabajo y justicia lo he dicho en mi primera exposición que ella se comprometía a ampliar

no solamente en la ley de cooperativas lo va a hacer evidentemente a la hora de elaborar esta comunicación se va a hacer

barrio antes que yo en las acciones

se han venido haciendo en esta cámara en el ámbito de la economía social nunca se ha actuado a espaldas del sector afectado y estoy segura que en este caso tampoco se va a hacer y por tanto tampoco pasa nada porque esté escrito o no esté escrito en realidad se va a hacer

se va a hacer exactamente igual señora

dentro de su iniciativa de la enmienda a la totalidad inicialmente presentada por ustedes prácticamente lo único que cambian es

en qué comisión se puede debatir evidentemente si la economía social está en el departamento de trabajo y justicia lo normal es que se debata

en otra el debate es el mismo que es lo importante y verdaderamente

no tiene mayor importancia y luego también

y luego como máximo va a estar aquí presentada la comunicación en el primer trimestre del dos mil dieciocho que ese es un plazo máximo puede ser menos ya estará elaborada la comunicación con lo cual la diferencia será

prácticamente la diferencia inexistentes y señora zabala creo que usted al final ha puesto como argumento bueno es que las ayudas se han disminuido pues no voy a dar

a la iniciativa de hoy que estamos hablando de la elaboración de una comunicación es que no tiene nada que ver esa argumentación con lo que hoy estamos hablando y con lo que hoy

los presupuestos porque este año no se ha disminuido la partida que se dedica a la economía social y al emprendizaje evidentemente ahora mismo no tengo los presupuestos y en un minuto

pero no se ha reducido sino que se ha aumentado con lo cual

como para decir esto que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando además lo tomo como excusa para no apoyar la iniciativa de hoy yo creo que no tienen nada que ver y además este año no se ha reducido sino que se ha aumentado con lo cual yo le animo a que se lo piense y vote a favor de la iniciativa porque los matices son tan

de diferencia entre la transaccional presentada con lo que ustedes presentaron también inicialmente y las argumentaciones que han dado que la diferencia no es casi nada y la diferencia con eh bildu es que no figura

figure o no figure recogido por escrito dentro

aipatuko dizuet esaten zuen entre el pasado donde están nuestros recuerdos y el futuro en el que tenemos nuestras ilusiones

heltzen diegu eta esaten dugu esa nueva relación que tienen ustedes con el pp esa nueva relación aquí las relaciones

gracias a que el pp les ha votado a su favor han sacado ustedes la transaccional que tenían con podemos

podrían ser trasparentes y publicar en los gaztetxez por ejemplo en cuanto a los dos argumentos fundamentales de que

ni los anteriores han hecho nada en materia de economía social

sin la colaboración y la presencia y la participación activa de los agentes

también tienen la suficiente capacidad como para dirigirse

es una relación en eso también bilateral porque los acuerdos suelen ser bilaterales

puede parecer una formalidad pero tiene su importancia y escudarse en que a mí no me ha llamado sí me ha llamado me parece que deberíamos de superar

en la política vasca a ese respecto porque viendo las diferencias que por ejemplo tenemos en este punto la verdad es que esto debería de aprobarse por

yo ayer cuando salí de este parlamento me informaron que era posible la entrada de podemos en nuestra transaccional y desgraciadamente esta mañana

no lo sé pero no me extrañaría que como decía la canción llegó el comandante y mandó parar

le voy a afear señora pinedo una expresión sí esa de la hermana fea de la economía

hubiera salido en todas las redes sociales como claro exponente del machirulo de la sociedad heteropatriarcal además de que no creo

que el gobierno trate este tema como la hermana fea que usted dice no

y ya que hoy en día los temas miden su importancia por la llamada transversalidad creo que este tema está siendo tratado también
desde un punto de vista transversal desde distintos departamentos del gobierno eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna